para llevar adelante todo esto los departamentos de educación y medio ambiente del gobierno vasco proporcionamos asesoría e formación

además de dos líneas de subvenciones económicas una para los centros y otra para los municipios también el profesorado de centros públicos de secundaria

de su docencia para dedicarlo a tareas de coordinación actualmente

esta es la razón por la cual la unesco en el marco de la década de la educación para un futuro sostenible dos mil cinco dos mil catorce ha reconocido a la agenda veintiuno escolar de euskadi

y nos invita a participar con las otras veinticuatro buenas prácticas seleccionadas en el congreso que se celebrará en japón el próximo noviembre y donde se definirá

en el que se basará el nuevo decenio que se está preparando dos mil quince dos mil veinticinco besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

el gobierno y el conjunto de las instituciones así como también otras organizaciones sociales pero en lo que es

estamos paliando esta situación a través de la renta de garantía de ingresos y el resto de ayudas sociales el total de unidades familiares perceptoras de la renta de garantía de ingresos en euskadi es de sesenta y cinco mil de estas veintiocho mil esto es el cuarenta y tres por ciento

o mujeres solas que tienen hijos e hijas a cargo son veintiocho mil familias a las que la solidaridad de la sociedad vasca

de la marginación y la pobreza y es una prioridad para este gobierno eskerrik asko lehendakari jauna urrea andrea zurea da hitza

el ochenta y tres por ciento del trabajo a tiempo parcial es realizado por las mujeres del total de personas que están en riesgo real

el ochenta y tres por ciento son mujeres del total de personas que se encuentran actualmente en situación de extrema pobreza el setenta y cuatro por ciento son mujeres el setenta y dos por ciento del trabajo reproductivo y de cuidados

para sostener la vida es realizado por mujeres estamos hablando de veintinueve por ciento del producto interior bruto

euros el noventa por ciento de las personas asalariadas sin contrato de trabajo son mujeres

víctimas de violencia machista una cifra que ha disminuido por la crisis el escaso presupuesto de emakunde tan solo seis millónes de euros el mismo importe que por ejemplo los uniformes de la ertzaintza cuesta

especialmente feminizados como la sanidad son los más azotados por sus políticas las políticas de cooperación claves para garantizar la equidad de genero y el empoderamiento de las mujeres

las trabajadoras del hogar siendo mayoritariamente mujeres especialmente personas migrantes

quienes no llegan en el ochenta y dos por ciento de los casos a cobrar el salario mínimo interprofesional trabajando sesenta horas diarias algo que es responsabilidad de este gobierno por no atender a las demandas de la asociación de trabajadoras del hogar en relación a la inspección por no hablar de las doce mil familias que se han quedado sin cobrar las ayudas a la conciliación

de renta es absolutamente contradictorio hablar de genero y a la vez acometer

miseria y a la precariedad ustedes con sus políticas están manifestando que las mujeres no somos una prioridad los recortes presupuestarios recaen directamente en nosotras y nos abonan el terreno para vivir una vida precaria

es como todo una cuestión de voluntad política señor urkullu le exigimos desde

a presentar unos presupuestos con perspectiva de genero para blindar las políticas sociales unos servicios públicos de máxima calidad y así de ese modo

y que las mujeres por fin podremos vivir una vida que merezca la pena ser vivida las mujeres en el centro y no los mercados como estamos viendo con las políticas de austeridad de este

señora urrea los discursos teóricos están muy bien atender a sesenta y cinco mil unidades familiares ayudando a mantenerse fuera de los umbrales de la marginación y la pobreza es la actuación de este gobierno de esas sesenta y cinco mil unidades familiares insisto

son familias formadas por mujeres solas o mujeres solas que tienen hijos e hijas

de la sociedad vasca ayuda a mantenerse fuera de los umbrales de la marginación y la pobreza mire lo que hace el gobierno vasco es garantizar cada mes

y hablo de la pobreza en general lo que hace el gobierno vasco es defender nuestro sistema de protección a pesar de las dificultades económicas y a pesar de los embates de quienes no creen en la solidaridad hacia las personas que pasan situaciones de dificultad tenemos que seguir poniendo en valor el sistema de protección que tenemos porque de él depende la calidad de vida de miles de familias y de personas

a miles de familias no queremos que las políticas sociales pierdan legitimidad por lo tanto debemos dejar de alimentar polémicas estériles dejar de decir medias verdades de utilizar la excepción como si fuera el todo dejar de hacer propuestas demagógicas diru sarrerak bermatzeko errentaren errealitatea ez da iruzurra ez da inor diskriminatzea

en el área de sanidad usted ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos y a la gran mayoría de los profesionales y también a una gran parte del público como paciente sin excepción consideran que la gestión de estos dos años ha llevado

a perder calidad en las condiciones laborales y por supuesto en atención al público y a los pacientes echan en falta en ustedes las convocatorias de empleo

bajas por incapacidades y jubilaciones la última ope se la recuerdo se hizo en la legislatura anterior la socialista

en culminar ofertas ya realizadas ahora en octubre dice que va a convocar una ope de trescientos plazas en este mismo año

y ahora nosotros le añadimos que visto el calendario es imposible que se pueda efectuar salvo que usted llame a convocar a que antes del treinta y uno de diciembre aparezca el pertinente anuncio en el boletín por eso le preguntamos cuándo va a convocar

para garantizar la prestación del servicio público a los ciudadanos eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

a todas las personas de euskadi esas personas que usted dice que yo he enfadado no han hecho todavía en esta legislatura ninguna huelga estuvieron todos los fines de semana durante tres meses todos los de huelga y hubo seis días

la legislatura anterior tenga usted un poquito de memoria señora roncal hace décadas que gracias

sería deseable no emborronar su buen nombre ganado día a día y con esfuerzo por hacer juego político desmemoriado

convocará la oferta pública de empleo que ha anunciado este mismo año eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

señor consejero no me tiene que responder a mí le tiene que responder a la ciudadanía y le tiene que responder a los trabajadores y de nuevo

no ha respondido usted a la pregunta cuándo va a hacer la ope de osakidetza cuándo va a hacer

no le sirve de nada utilizar recursos como que no puedo no me dejan el diez por ciento de la tasa de reposición oiga usted no tiene voluntad de hacer una ope

que no le hayan hecho una huelga no significa más que que son hiper responsables

una mejor atención a la ciudadanía y que nos hicieron huelga ya lo creo que sí incluso antes de tomar posesión en el gobierno o sea que eran huelgas políticas

no como respuesta a condiciones laborales equivocadas o mal

y además tengo que decirle que usted contaba con un respaldo político puesto que ya le ofrecimos en abril la posibilidad de hacer ope

recibió una ope que solo tenía que gestionarla pero como políticamente no le interesaba finalizarla hasta esa la emborronó y lo que hizo fue en realidad comprometer a los trabajadores que han tardado muchísimo más tiempo en poder tener un empleo estable

su preocupación fundamental de ofrecer una sanidad pública de calidad oiga no se puede ofrecer un servicio de calidad con una población con unos trabajadores

de su puesto de trabajo y que están cambiando cada dos por tres porque usted sabe muy bien que los contratos eventuales son cada vez más cortos más corto el período de tiempo y de dedicación laboral por tanto haga usted una ope
consiga usted una plantilla estable que pueda realmente formarse eskerrik asko roncal andrea denbora amaitu da

señora roncal por poner un período reciente desde mil novecientos noventa y cinco

seis ofertas públicas de empleo una ope cada tres años

precisamente no más ágiles que las anteriores y está usted preocupada mire

cuántas comunidades autónomas gobernadas por el partido socialista han consolidado empleo en sanidad

pero reflexione sabe lo que ocurre que usted no está en hacer oposición usted está en decir que todo esta mal pero el sistema sanitario tiene un termómetro diario los ciudadanos y ciudadanas

este gobierno tiene un compromiso firme con el empleo público y trabaja para consolidarlo a través de ope periódicas ofertas públicas de empleo transparentes y con igualdad de posibilidades para todas las personas que se presentan porque en un momento como el actual el que el empleo es un bien escaso una ope pública supone una expectativa de consolidación

lor dezaten como le decía llevamos meses trabajando en más de una oferta pública de empleo

en este ámbito como usted conoce bien no tenemos facilidades y para consolidar un número de empleos

se ha generado por el partido popular un escenario normativo bastante complejo que requiere de un análisis sobre los pasos a dar para ofrecer seguridad jurídica

de una ope lleva procedimiento y tiempo usted debería saberlo

se está trabajando en nuevos procesos de ope en plural de ope pero para nosotros es muy importante que los representantes de los trabajadores tomen parte en un proceso de tanta trascendencia si no

que se convocó sin ningún acuerdo sindical y concluyo este gobierno tiene un firme compromiso con osakidetza y con la estabilidad de sus trabajadores

muchas gracias señora presidenta señor consejero esta misma semana

en el que se adoptan dos medidas una la previsión de cierre de los ingresos para este año y dos la previsión de ingresos para el ejercicio que viene

para los presupuestos de todas las administraciones vascas no solo del gobierno vasco sino también de las diputaciones y también de los ayuntamientos porque aquí va todo en cascada a nosotros nos ha sorprendido un poco la previsión de cierre no le voy a hablar de la previsión de ingresos del año que viene porque todavía estamos en el dos mil catorce y nos ha sorprendido un tanto que se diga que se va a cumplir exactamente la previsión de ingresos prevista hace un año y se lo digo porque en fin nuestras dudas podemos tener pero además

no entendemos cómo se puede cumplir esa previsión porque si se cumple esa previsión pues prácticamente todos los planes que nos ha presentado el gobierno vasco

y por lo tanto nosotros la pregunta que le hacemos es a la vista de estos datos para este año

la respuesta del gobierno para financiar esos planes

a mí me cuesta creer que cuando la recaudación en el mes de septiembre de la diputación más importante que aporta más del cincuenta por ciento la real

pero se lo acepto a esa diputación y a usted yo lo que le quiero decir es lo siguiente

se hicieron unas previsiones de ingresos después qué ha ocurrido y ya le digo que acepto algo que me es complicado de comprender cómo se puede hacer pero se lo acepto

que ha habido una subida de impuestos que se pactó que iba a suponer una mayor recaudación ha ocurrido que había un plan de lucha contra el fraude fiscal

qué ha ocurrido que se han concertado cinco nuevos impuestos que supuestamente nos tenían que dar una mayor recaudación qué ha ocurrido que usted mismo

para la comunidad autónoma para este año y no se traduce y nada de todo eso se traduce en mayor incremento de recaudación nada

le pongo un ejemplo este es el plan de industrialización dos mil catorce dieciséis

en función de las evoluciones de los ingresos presupuestarios con los que pueda contar la tesorería permitirá al plan dotarse de recursos adicionales segunda pata

es que es ninguno es que la previsión del gobierno que se ha acordado

es decir después de todo lo que ha pasado desde aquella previsión resulta que como usted dice por unanimidad de todo el mundo se dice que no vamos a tener ni un euro de ingreso más y a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho porque sí hemos visto

legislatura de este año se han ido haciendo recortes sociales
y yo ya sé qué partidas incluso han desaparecido pero la pregunta que le hago es qué piensan hacer eskerrik asko damborenea jauna denbora amaitu zaizu

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari le pregunto por unas declaraciones realizadas por el señor bilbao que a mí y a otra mucha gente nos han resultado ciertamente sospechosas

normales pero a upyd y a otros muchos partidos políticos nos ha parecido

ciertamente sospechosas porque el señor bilbao en el último pleno de

a los presentes y a los ausentes que pueden estar tranquilos porque nunca escribiré mis memorias memorias en las que podrían aparecer personas con sus grandezas y sus grandes miserias desgraciadamente habría muchas miserias

y la contraria en público los que mentían sabiendo que mentían los que sabían que nosotros teníamos información que no podíamos utilizar en su contra y jugaban con ello

los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres

e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer y lo que está bien o mal a todos ellos que saben perfectamente quienes son les digo que pueden estar tranquilos porque nunca escribiré mis memorias yo le pregunto como representante de los ciudadanos vascos de qué cree que habla el diputado general

cree usted qué está amenazando a alguien quiénes son nosotros que teníamos información

en su contra quiénes hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen por qué les promete que no contará nada qué sabe que los ciudadanos no sepan o no sepamos quiénes tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales señor lehendakari se refiere exactamente el diputado general quiénes han repatriado dinero de origen desconocido

lo que tienen que hacer o lo que está bien o está mal en fin qué pretende encubrir según usted el señor bilbao qué es exactamente lo que está tapando de qué es exactamente de lo que está hablando yo creo que su respuesta como representante de los ciudadanos vascos interesa mucho al conjunto de la sociedad gracias

egun on guztioi lehendakari eta legebiltzarkideok señor maneiro como usted ha llevado este asunto a la fiscalía yo creo que lo mejor que podemos hacer es recordar las palabras que a este respecto pronunció inmediatamente después de que usted

cuando se le preguntó sobre el particular abro comillas me dio la sensación de que fue un comentario totalmente político en un pleno de juntas generales

pero no conocemos la opinión del señor lehendakari que no ha querido dar su opinión en relación a esta cuestión que a nosotros nos parece escandalosa que es un comentario político evidentemente

es decir qué está ocultando a qué se refiere nosotros pensamos que son declaraciones ciertamente sospechosas habla de fajos de billetes

desconocido habla de señores que van por la calle diciendo lo que tenemos que hacer y además termina diciendo que pueden estar tranquilos porque no va a contar nada

en paraísos fiscales o dinero repatriado de origen desconocido no sé si están ustedes muy acostumbrados a ver tanta corrupción y tanto fraude lo razonable

las expliquen al conjunto de la ciudadanía nosotros a diferencia del señor bilbao no queremos que los corruptos estén tranquilos sino justo lo contrario

quiere que los corruptos y los que han cometido fraude estén tranquilos como el señor bilbao eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

andrea señor maneiro después de su relato fantástico muy propio del drama épico

vamos a volver a la prosa estrictamente política si usted ha recurrido a la fiscalía

las minorías minoritarias de esta cámara que quieren hacerse notar y no tienen otra posibilidad si hubiese obtenido usted una representación en las juntas generales de bizkaia pues podría haber solicitado la comparecencia en cualquier caso tengo entendido que el propio josé luis bilbao ha dicho que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante las juntas generales ni tampoco

declaraciones ante la fiscalía en el supuesto de que la fiscalía le convoque para hacerlo pero es que la prosa realmente va muy lejos de lo que usted esboza así como posibilidades en este asunto fíjese decía

los servicios de la hacienda foral han actuado siempre de acuerdo con la ley y han denunciado ante la fiscalía todos los casos en los que se ha detectado un ilícito penal literal y añade yo no he encubierto a ningún delincuente

cada vez que ha sido detectado un posible ilícito penal este ha sido denunciado ante las autoridades competentes

hicieron que el fiscal superior de la comunidad autónoma concluyera también literal yo aquí no estoy especulando sino reproduciendo literalmente sus palabras pensé

que probablemente en su momento habría remitido a los juzgados eso es lo que pensó y además confirmó de hecho

ha presentado varias denuncias son palabras del fiscal superior bien mire yo no sé cuál será la evolución de este caso no sé si finalmente

de que ante la fiscalía tendrá más derechos y más garantías que las que los militantes de upyd que discrepan de la dirección la tienen

de lo que es ser disidente en la organización en la que usted participa son terribles seguro que tenga o no que comparecer tendrá más garantías y en fin me remito a lo dicho sus palabras son clarísimas son inequívocas

siempre ha hecho una lectura parcial de sus intervenciones habló de lo que dijo en las juntas generales y no de las aclaraciones posteriores que yo creo que son inequívocas que son clarísimas

al fiscal superior de la comunidad autónoma a extraer las conclusiones que acabo de citar que yo comparto plenamente usted me ha dicho qué opina usted mire yo en este punto

exclusivamente políticas en un pleno de juntas generales sin más trascendencia

hablamos de publicidad institucional ilegal promovida y acordada por el gobierno vasco para financiar irregularmente a medios de comunicación y amigos del partido nacionalista vasco lo cierto es que de este asunto ya hemos hablado en algún pleno de este parlamento

en la diputación permanente del parlamento vasco se aprobó con el voto favorable de todos los grupos políticos de la oposición la siguiente enmienda de transacción

cinco punto tres de la ley seis barra dos mil diez de publicidad y comunicación institucional que establece expresamente que la publicidad institucional no debe

ni por inexactitud de datos ni por omisión o cualquier otra circunstancia dos el parlamento vasco

para reestablecer la legalidad vulnerada y importante recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta tres

promocionar o difundir campañas institucionales que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora

el parlamento vasco denuncia la vulneración de un artículo concreto del código ético y de conducta del gobierno vasco

en relación con el destino de recursos públicos para la compra de espacios de noticias reportajes o entrevistas para

y propaganda del gobierno contraviniendo claramente la legalidad la enmienda de transacción ya digo fue apoyada por todos los grupos de la oposición y el gobierno vasco y el lehendakari en nuestra opinión tienen que cumplirla está en la obligación por lo tanto de cumplir cada uno de estos puntos

en concreto los pasos necesarios debe dar el gobierno para recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta yo le pregunto señor lehendakari por el conjunto de medidas y decisiones que piensa tomar en todo caso esta transaccional aprobada

cinco casos que afectan a cuatro departamentos del gobierno vasco educación salud osalan también

todo esto que hemos denunciado y que hemos llevado efectivamente a los juzgados suma noventa y tres mil setenta euros no la cuantía que usted utiliza y que es inferior a esta hablamos de noventa y tres mil setenta euros hablábamos de cinco casos

del gobierno vasco que demuestran claramente que el gobierno su gobierno financia de manera ilegal a determinados medios de comunicación amigos suyos para lograr básicamente dos cosas pero sobre todo la primera que es financiarlos irregularmente

habitualmente evidentemente defienden siempre las posiciones del gobierno vasco y critica las posiciones de los partidos de la oposición pero en todo caso ahí están

oso larriak dira por lo tanto teníamos cinco casos distribuidos en cuatro departamentos pero tenemos ya siete nuevos

por upyd donde efectivamente queda perfectamente claro que se vulnera la ley de publicidad institucional lo cierto es que en su momento tal como

presentamos veinticuatro nuevas solicitudes de información a los distintos departamentos del gobierno y hemos podido detectar como decía siete nuevos casos que vulnerarían la ley de publicidad institucional todos ellos se refieren al grupo noticias y el importe total de estos contratos sumaría ya

euros me refiero a los siete últimos casos en estos contratos están implicados los departamentos de educación empleo y políticas sociales

medio ambiente y política territorial administración pública y justicia y desarrollo económico y competitividad el asunto todavía no ha terminado porque en otros trece casos que afectan todos ellos a la emisora onda vasca también del grupo noticias

no nos ha querido enviar los audios para que nosotros podamos comprobar si efectivamente se vulnera o no la ley de publicidad institucional el importe

a estos trece casos es que el gobierno no quiere enviarnos toda la información

es decir que pretende ocultar pruebas en estos casos de ocultación están implicados todos los departamentos del gobierno vasco excepto el departamento de seguridad como decía antes estas prácticas irregulares se suman a las que ya denunciamos hace meses en proceso judicial efectivamente la denuncia fue admitida a trámite recordemos que se trataba de varios contratos de los departamentos de educación salud

por lo tanto ha día de hoy ya podemos decir que estamos hablando de una práctica generalizada en la que estarían implicados todos los departamentos

según la información de la que disponemos todos los departamentos del gobierno vasco han vulnerado la ley de publicidad institucional vasca todos los departamentos está todo el gobierno ya implicado en este gravísimo asunto y le recuerdo cuales son los posibles delitos

y malversación de fondos públicos yo no sé por qué el señor erkoreka sonríe tanto públicamente porque me cuentan me cuentan y es normal además que el gobierno vasco está seriamente preocupado por este asunto

están afectados todos los departamentos hay serios indicios de comisión de delitos

como que sonríen están tranquilos porque están seriamente preocupados porque les hemos pillado y ya digo son doce casos ya seguros en los que el gobierno vulnera la ley de publicidad institucional ilegalidades

graves en fin no voy a explicar pormenorizadamente en qué se basan estos siete nuevos casos ustedes los conocen perfectamente pero suman casi ciento cincuenta mil euros que sumados a los anteriores hacen un total

qué opinión le merece esta cuestión señor lehendakari cómo ve el asunto está usted tan preocupado como me cuentan o piensa que

de este asunto qué ocurrirá cuando

o incluso consejeros del gobierno vasco qué ocurrirá cuando determinados miembros del gobierno vasco llegue incluso a ser imputados

habrá que esperar para comprobar si es así en todo caso sí parece que puede ser así señor lehendakari parece que puede ser así porque en nuestra opinión los delitos son evidentes y las pruebas también que le parece esta cuestión señor lehendakari

en general qué le parece este comportamiento del gobierno y en concreto si piensa cumplir la transaccional que fue aprobada en la diputación permanente de este parlamento hace tres meses va a cumplir esa transaccional o como en otros tantos casos va a obviar las exigencias

sí como en tantos otros casos va a obviar las exigencias de este parlamento gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

búsquese unos informadores mejores en lo que respecta a la tranquilidad o el nerviosismo o la preocupación que yo por este caso pueda tener

en cualquier caso permítame comenzar mi respuesta diciendo que el gobierno vasco ha adoptado todas las medidas y decisiones que yo

en mi comparecencia ante la diputación permanente el pasado día siete de julio son cinco compromisos propios que paso a desarrollar anuncié en primer lugar

y dije textualmente vamos a ampliar la información remitida a este parlamento en lugar de un informe anual con los gastos de publicidad remitiremos a partir de ahora un informe cada cuatro meses

este compromiso señor maneiro se ha cumplido el gobierno habrá remitido ya hoy mismo a este parlamento la información correspondiente a los nueve primeros meses de este año usted podrá decir luego que upyd ha destapado no sé cuantos casos

quiero recordarle que es la primera vez que esta información se remite con este nivel de transparencia desde la aprobación de la ley de publicidad el año dos mil diez el gobierno vasco está enviando la información detallada y completa

incluyendo el desglose de todos los patrocinios el segundo compromiso tiene que ver con la mejora del procedimiento interno y dije también textualmente hasta la fecha los patrocinios no han sido planteados y aprobados por la comisión interdepartamental de publicidad a partir de ahora

bien este compromiso está cumplido esta comisión se ha reunido los días diecisiete de julio quince de septiembre y catorce de octubre todas las propuestas de patrocinio se han presentado y aprobado en estas reuniones el tercer compromiso tiene que ver con el control

he dado instrucciones a la comisión interdepartamental de publicidad para que sean analizados todos los patrocinios que hayan podido inducir a error o confusión bien los patrocinios cuestionados han sido analizados por la comisión y desde luego todos los que puedan ser cuestionados en el futuro también lo serán

también dije textualmente se ha solicitado a la comisión del código ético y buen gobierno un informe específico sobre esta materia de hecho

una por parte del gobierno y una segunda por parte del parlamento ambos informes señor maneiro han sido ya emitidos y se encuentran a su disposición

y el quinto compromiso tiene carácter institucional y dije también textualmente dado que se ha anunciado un procedimiento judicial

el procedimiento judicial está abierto y hasta la fecha el gobierno ha remitido toda la documentación que se le ha solicitado y quiero dejar clara constancia de que el gobierno ha cumplido todos y cada uno de los compromisos adquiridos por sí mismo ante este parlamento legebiltzar honen aurrean uztailaren zazpian onartu nuen

bien dicho lo anterior y téngase la referencia que usted varias veces ha hecho mencionando expresamente publicidad institucional ilegal usted ya la ha calificado además de hablar de la financiación ilegal irregularidades ustezko delituak eta abar usted me interpela en relación a la enmienda transaccional aprobada en este cámara

todos los patrocinios realizados por el gobierno vasco se han ajustado al procedimiento ordinario para la realización de contratos todos estos contratos han sido debidamente aprobados por los controles presupuestarios y de legalidad internos

los dos informes de la comisión de ética pública no establecen en modo alguno que se haya producido vulneración de ley usted conoce el informe señor maneiro de la misma manera que yo permito que obviamente usted pueda sonreírse ante mis exposiciones a usted le preocupa que el resto de la cámara se pueda sonreír ante sus exposiciones

se ha podido hacer porque usted conoce el informe de la comisión de código ético usted lo conoce señor maneiro pero se lo voy a leer literalmente

para considerar que en el ámbito de la publicidad y la comunicación institucional

ante un incumplimiento consciente y deliberado de la regla ética básica que impone a los cargos públicos la observación de la ley tercero y en cualquier caso

le corresponde establecer si se ha producido o no algún tipo de vulneración de la legalidad el gobierno es el primer interesado en el rápido esclarecimiento de esta cuestión en relación al segundo punto y la recuperación del dinero público es muy importante recordar que todos los contratos suscritos por el gobierno con los medios de comunicación se han cumplido de manera íntegra la inversión realizada por el gobierno ha tenido su reflejo en los medios de comunicación reitero que estos contratos han seguido los procedimientos administrativos y han contado con los consiguientes

y de legalidad internos en cualquier caso señor maneiro el gobierno ha solicitado un informe jurídico que determine si en la situación actual

es legalmente viable avanzar en la resolución aprobada en el parlamento en relación al tercer punto el gobierno es el primer interesado en que todo patrocinio

por parte del medio de comunicación respectivo este compromiso de seguimiento y control se ha intensificado a partir del día siete de julio del presente año la comisión interdepartamental de publicidad analiza todos los casos

en relación a los mismos y en cuarto lugar usted que tan acostumbrado está a hablar de depuración de responsabilidades señor maneiro en relación a la responsabilidad el gobierno cuenta con tres referencias a la hora de establecer su posición el control administrativo interno el dictamen

y obviamente la resolución judicial reitero por lo tanto que corresponde a la justicia dilucidar si se ha actuado contraviniendo la legalidad

señor maneiro corresponde a la justicia a la que usted ha recurrido eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí señor lehendakari yo le quiero decir en primer lugar que estos casos son casos que han sido destapados
como consecuencia de que hemos preguntado y repreguntado hasta comprobar efectivamente que se vulneraba la ley de publicidad institucional esta es la realidad que hemos tenido que

pero nosotros lo hemos hecho sí por lo tanto hablamos de cinco casos ya conocidos y siete nuevos yo quiero

un autor sin ninguna referencia que es publicidad pagada por el gobierno vasco sin ninguna referencia que es publicidad pagada por el gobierno vasco

euros reportajes del departamento de empleo y políticas sociales sobre servicios sociales en deia

diario de noticias de álava ocho mil euros más iva y diario de noticias de gipuzkoa

hay varias entrevistas a miembros del gobierno lo cual es extraordinariamente grave en el deia no se hace ninguna referencia a que es publicidad en otros medios se dice página especial o en algún caso publicidad pero no se dice exactamente

institucional del gobierno vasco esto vulnera claramente la legislación vigente reportajes del departamento de educación sobre ciencia e investigación en deia ocho mil euros diario de noticias de álava casi ocho mil euros y diario de noticias de gipuzkoa casi ocho mil euros con varias

no nos envían tampoco todas las copias por lo que hemos visto hay varias entrevistas pagadas reportajes del departamento de seguridad sobre emergencias en deia diario de noticias de álava y diario de noticias de gipuzkoa importe global casi veinte mil

pagada esto vulnera claramente la ley de publicidad institucional reportajes de doble página del departamento de medio ambiente piensa en verde

esto vulnera claramente la ley reportajes de doble página del departamento de administración pública y justicia

pero solo se nos ha adjuntado las copias de deia ninguna referencia a que es publicidad pagada se incluye aquí también y esto es extraordinariamente grave

a un viceconsejero el gobierno paga a determinados medios de comunicación para que estos medios entrevisten a miembros del gobierno esto es un autentico escándalo esto es una vergüenza que el gobierno pague a determinados medios para financiarlos a cambio de que

del gobierno esto es muy grave y ustedes saben que es muy grave y saben que les hemos pillado porque hemos hecho ese trabajo de analizar toda la documentación

y por eso está admitida a tramite la denuncia por esos mismo porque es bastante evidente

de la empresa vasca en los audios adjuntados se comprueba que no hay ninguna referencia a que son programas pagados o promocionados por el gobierno vasco señor lehendakari

los delitos son graves y hay trece casos de solicitud de información tanto que habla de transparencia que no nos adjunta la información que pedimos pedimos los audios de esas entrevistas de esos programas y no se nos entregan han destruido ustedes pruebas

por qué no se nos han entregado esos audios podríamos estar ante trece nuevos casos que vulnerarían la ley de publicidad institucional esta es la realidad más allá de lo que diga la comisión de ética que por cierto habla de incumplimiento de la ley que no se da de manera deliberada y consciente esto es lo que dice pero en todo caso independientemente de lo que diga el comité yo sé lo que dice la ley

y oído y ustedes tienen que hacer todo lo posible para recuperar ese dinero ese dinero entregado a sus amigos la propia consejera de educación se comprometió en una comisión a estudiar esa posibilidad porque se había dado cuenta efectivamente

asumir por lo tanto esa responsabilidad que todos los que han llevado a cabo estas actuaciones asuman su responsabilidad esto es lo que nosotros pedimos nosotros en próximos días presentaremos una nueva denuncia ante los juzgados

nuevos casos estamos hablando ya de doce nuevos casos señor lehendakari es muy grave eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

para que algo sea delito tiene que ser deliberado y consciente

mire yo conozco muy bien la enmienda transaccional que fue aprobada en el parlamento y la respeto plenamente la enmienda transaccional habla en sus dos primeros puntos además

vulneración del artículo cinco punto tres y vulneración también de manera reiterada posteriormente

y anuncia que va a denunciar también los casos al juzgado ya le he respondido en la primera intervención

y que por lo tanto no se erija usted en juez y verdugo no yo conozco insisto la

lo que no tengo tan claro es que usted escuchará las explicaciones que yo mismo ofrecí aquel mismo día el día siete de julio en esta cámara y no tengo claro que usted asuma tampoco que el gobierno

escrupuloso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos el propio gobierno señor maneiro y no tengo claro de que sea capaz de aceptar la evidencia de que estamos siendo totalmente transparentes que ustedes destapen los casos que ustedes hagan no sé qué ejercicio de investigación me parece muy bien pero reconozca la transparencia con la que está actuando este gobierno

y aquellos datos que no posee y no puede aportar información está justificado y está argumentado señor maneiro ezagutzen duzue jaurlaritza gardenaren aldeko nire konpromisoa eta

pero señor maneiro reconozca también que el gobierno responde pero constato que no escucha o que no toma en consideración las explicaciones que se le ofrecen

entre lo que es publicidad institucional y lo que es patrocinio ahora bien lo que ya es incomprensible es que usted solicite un dictamen a la comisión de ética pública usted

y se lo voy a leer literalmente porque el acuerdo nueve barra dos mil catorce

dice al respecto de la resolución aprobada por el parlamento que y cito textualmente incluye afirmaciones sobre el empleo presuntamente irregular de recursos públicos en el ámbito de la publicidad institucional

que solo podrían darse por acreditados de una manera fehaciente mediante la práctica de pruebas de carácter contradictorio en el seno de un procedimiento judicial

usted no atiende estas razones y vuelve a reiterar que se debe recuperar el dinero yo me baso en los principios de legalidad y le digo que una proposición no de ley una enmienda transaccional como la aprobada el día siete de julio es

pero no es título suficiente para reclamar la devolución de unos pagos que se han realizado en el marco de contratos legalmente formalizados

esta determinación está en manos del tribunal y su resolución que confiamos se pueda producir a la mayor brevedad para la total clarificación de esta cuestión

usted ha pedido mi comparecencia en el parlamento he comparecido y le he dado todas las explicaciones requeridas usted ha pedido un informe a la comisión de ética pública

usted ha llevado este tema ante el juez y los tribunales lo están analizando

le ha dicho a usted que eso lo dictaminará el procedimiento judicial que ha abierto usted mismo está claro usted no necesita

ni informes de la comisión de ética pública ni decisiones judiciales usted ya ha juzgado ha declarado culpable y además ha condenado usted no escucha porque a usted le gusta el ruido y cuanto más ruido mejor con el único objeto de desprestigiar y condenar sin sentencia previa señor maneiro

gracias presidenta no sé exactamente quién me va a responder pero yo le pregunto a usted señor lehendakari

si sabe usted cuáles son las funciones que deben cumplir los medios públicos de comunicación y si efectivamente considera que la actual e i te be cumple esas funciones o no nosotros pensamos que en absoluto si la actual e i te be

informativa la neutralidad ideológica el respeto al pluralismo político la veracidad o todos esos principios que están perfectamente recogidos en la ley de constitución del ente si usted considera que la actual e i te be cumple perfectamente

de momento ya sabemos que hay una inmensa mayoría de grupos políticos en concreto todos los grupos de la oposición que directamente lasemana pasada dijeron a la actual directora general de e i te be que en absoluto

de un modo u otro le dijeron a la actual directora general de e i te be señora iturbe que e i te be se ha convertido y es

un instrumento al servicio del gobierno vasco y al servicio del partido nacionalista vasco cada grupo hizo su intervención concreta

expuso cuál era su opinión al respecto pero todos coincidimos en que e i te be es un utensilio al servicio del gobierno vasco y al servicio del partido nacionalista vasco esto es lo que todos dijimos señor

en fin usted piensa que la actual e i te be dirigida por la señora iturbe cumple esas funciones para las que se supone que existe nosotros pensamos que no tal como he dicho

pero en concreto al servicio particularmente del partido nacionalista vasco egungo eitb eaj eta gobernuaren tresna besterik ez da zuen

y qué ha sido e i te be una televisión nacionalista para nacionalistas un ente que tiene como objetivo convertir a los ciudadanos vascos en nacionalistas vascos que traslada una visión parcial de la sociedad vasca

sectaria y que no responde en absoluto al interés general del conjunto de la sociedad en el caso de upyd esto lo llevamos denunciando desde hace año y medio antes también pero lo cierto es que

desde hace año y medio todo esto está quedando mucho más en evidencia

de infinidad de cuestiones que afectan a esta cuestión desde el propio mapa del tiempo de los informativos de e i te be donde se incluye

navarros ciudadanos del sur de francia y vascos de la comunidad autónoma formamos parte de una misma comunidad política podemos hablar de los informativos convertidos en monográficos de la causa nacionalista de la causa y el programa nacionalista con permanentes informaciones relativas a todo lo que importa al mundo nacionalista presos de eta

temática nacionalista el conflicto político en fin el programa político del partido nacionalista vasco y del mundo nacionalista es lo que

en todos los informativos de e i te be incluidas informaciones relativas a lo que ocurre en navarra y el sur de francia aunque no ocurra nada relevante

al sur de francia iparralde y algo referido a navarra incluso anteponiendo esas informaciones a lo que ocurre en este propio parlamento nosotros lo hemos visto de manera permanente y eso y tiene un objetivo convertir a los ciudadanos ciudadanos nacionalistas vascos y todo esto mientras se oculta en fin se pospone o se reduce la información que pueda perjudicar al partido nacionalista vasco

de ibarzaharra la publicidad institucional ilegal promovida por el gobierno vasco o cualquier otra cuestión que resulte incómoda al partido nacionalista

de los informativos de e i te be y de los programas habituales y de las distintas tertulias o se reducen a la mínima expresión nada que pueda incomodar

de una manera vendible para la causa nacionalista en fin respecto a los programas de debate tertulias y demás exactamente lo mismo o peor

los presentadores son nacionalistas en su inmensa mayoría y no lo disimulan en absoluto los moderadores no son moderadores sino que forman parte

como si fueran opinadores como los demás nacionalistas la presencia de personas que no piensan en clave nacionalista es ínfima

basta con ver la etb tanto en castellano como en euskera aunque posiblemente especialmente en euskera donde el bochorno que produce es ciertamente

ya digo moderadores que no son moderadores sino que con sus preguntas con sus afirmaciones con sus palabras con sus hechos con sus gestos lo que hacen es defender la causa nacionalista produce un gran sonrojo y es cierto que los ciudadanos no nacionalistas están abandonando

o escuchar e i te be porque consideran que no es la suya sino que consideran que lo que finalmente es es una radio una televisión al servicio del partido nacionalista vasco evidentemente no estamos hablando solo de la distribución de los tiempos

o de la temática sobre la que se insiste estamos hablando de los tiempos dedicados a cada partido político estamos hablando de los tiempos también

en general estamos hablando de cómo se tratan los temas estamos hablando del momento en que se tratan los temas estamos hablando del lenguaje empleado estamos hablando del modo de contar lo que se cuenta estamos hablando de los presentadores de los moderadores entre comillas

y las preguntas que se realizan en esas tertulias o en esos programas de debate es un cúmulo por lo tanto de circunstancias basta con ver o escuchar para que sepamos perfectamente de qué es de lo que estamos hablando para e i te be españa es un país extranjero y el estado

a los vascos solo nos representan o el pnv o amaiur

e i te be los demás no existimos los demás debemos ser extranjeros a nosotros los ciudadanos vascos en fin según e i te be nos representa

o amaiur imposible ver ni una sola declaración de nuestros representantes en el congreso de los diputados imposible absolutamente imposible en fin qué decir de las víctimas del terrorismo no existen ni ellas ni sus

todo en ultima instancia para beneficiar al nacionalismo y en concreto al gobierno vasco y al gobierno del partido nacionalista vasco y al partido nacionalista vasco

pagar los ciudadanos vascos como para permitirnos el lujo de que nuestro dinero se destine a defender la causa del nacionalismo

hau aldatu behar dugula de ahí la interpelación que realizábamos sobre los propósitos del gobierno para hacer que e i te be cumpla las funciones que debe cumplir una radio televisión pública qué es lo que piensan hacer dejar todo como está van a atender los requerimientos de la oposición

atender las quejas planteadas también en la comisión desarrollada la semana pasada o van a actuar del modo en que lo hizo esta directora general de e i te be en esa comisión atacando incluso a los grupos de la o posición

qué es lo que van a hacer a partir de ahora gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

como bien sabe e i te be se crea en mil novecientos ochenta y dos como un servicio público esencial y como un instrumento capital para la información y participación de la ciudadanía vasca

egin ahal dezaten y en su artículo tercero afirma que la actividad de los medios de comunicación social cuya titularidad corresponda a la comunidad autónoma del país vasco se basará en los siguientes principios objetividad veracidad e imparcialidad de las informaciones me voy a permitir detenerme en este punto un poco una objetividad veracidad

que se van a dar a conocer el contraste por distintas fuentes y una imparcialidad que significa que los informadores serán imparciales es decir no se adhieren

jarraitzen dut hirugarren atal honekin la distinción y separación entre información y opinión

igual tratamiento diferenciado y separado requerirá la publicidad comercial berdintasun printzipioari begirunea politika erlijio gizarte

que crear un espacio de comunicación propio poner el medio al servicio de la sociedad vasca y particularmente para contribuir a la promoción del euskera son objetivos que establece la ley objetivos que tienen un amplio consenso social y político hirugarren atal hau gida liburu bilakatu zaio

los criterios o principios empleados para el tratamiento de la información están bien definidos en la ley de creación del ente y por supuesto es función y obligación de la directora general del ente cumplir y hacer cumplir tanto lo dispuesto en esta ley de creación del ente público

me consta que e i te be aplica estos criterios y otros más en la elaboración de la información señor maneiro e i te be no está es más no debe estar a servicio de ninguna ideología concreta ni a la que usted

pero sin embargo desde el punto de vista profesional y de la gestión de la información la dirección de e i te be dispone de la necesaria autonomía

pero de todas formas señor maneiro es cierto que el trabajo periodístico no siempre es infalible

toca sencillamente reconocerlos analizarlos y adoptar los protocolos preventivos necesarios para evitar su repetición y lo manifiesto con absoluta sinceridad

señora consejera su respuesta es un desprecio y un insulto al trabajo parlamentario usted ha dicho básicamente dos cosas que apoya a la directora general de e i te be señora iturbe está de acuerdo con ella

porque defiende los postulados nacionalistas y luego lo que ha hecho ha sido leernos la ley y yo creo que este parlamento tiene que dar más de sí no puede ser que una consejera cuando se le hacen preguntas concretas y se analiza creo que de manera rigurosa la situación y el trabajo diario de e i te be yo creo que es razonable exigir algo más a la señora consejera

de verdad usted piensa que estamos hablando de errores puntuales cometidos por e i te be en absoluto estamos hablando de una estrategia de e i te be y del propio gobierno para que e i te be defienda al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco no estamos hablando de errores puntuales

los temas le he hablado del trabajo que realizan los supuestos moderadores en las diferentes tertulias le he puesto infinidad de ejemplos le he hablado del lenguaje que utilizan los moderadores y los presentadores le he hablado de muchas otras cosas y usted viene aquí a leernos

el trabajo de la señora iturbe de verdad piensa que la actual e i te be cumple esos principios de objetividad neutralidad pluralidad y veracidad si es así es de las pocas que lo piensan así

sí todos los grupos de la oposición se lo dijimos la semana pasada a la señora

al servicio del partido nacionalista vasco todos los grupos de la oposición cada uno con su punto de vista coincidió en este asunto fundamental un instrumento al servicio del partido nacionalista vasco usted tuvo ocasión de escuchar o ver la comparecencia de la señora iturbe

vio como respondió a los grupos vio qué se dedicó a atacar a los grupos políticos e incluso dio opiniones políticas en relación

razonable que en lugar de explicarse y en fin explicar

se dedique a atacar de manera prepotente a los grupos de la oposición

creo que su respuesta a la espera de la réplica me parece un insulto al trabajo parlamentario me parece absolutamente

sea leer la ley de creación de e i te be y que no explique nada más que eso y que no planteé argumentos a los argumentos planteados por un servidor es ciertamente lamentable le he hablado que efectivamente en los informativos y en esos programas se habla exactamente de lo que interesa

al mundo del nacionalismo y he explicado también que hay determinados asuntos turbios relacionados con el partido nacionalista vasco que nunca aparecen en esos informativos y en esas tertulias porque hay una predisposición previa para proteger los intereses del partido nacionalista vasco y usted me habla de errores puntuales

creo pensar y creo que hay una mayoría de este parlamento que ya rechaza absolutamente el papel que está ejerciendo la señora lo veremos en todo caso en dos semanas vamos a presentar una moción para pedir el cese de la directora general de e i te be esto es una absoluta vergüenza

sea un instrumento al servicio del partido nacionalista vasco son cien millónes de euros lo que cuesta anualmente no puede ser que ese dinero público se dedique a sus

y por lo tanto vamos a proponer su cese vamos a proponer su cese porque ya ha llegado demasiado lejos la situación es inaceptable es insoportable

amplia en este parlamento que le diga al gobierno que proponga su cese inmediato creo que es una necesidad para la sociedad vasca disponer de unos medios públicos de comunicación dignos y que cumplan todos los requisitos que están perfectamente señalados en esa ley que usted
ha venido a leernos eskerrik asko maneiro jauna

de los aspectos citados por usted ya han sido tratados en esta cámara

el volver a recordar cual es la ley de creación del ente sea ninguna ofensa para esta cámara por lo menos no era mi intención

por supuesto tampoco pienso que todo lo que usted ha presentado responda a ninguna estrategia

objetividad veracidad imparcialidad distinción entre información y opinión igualdad

cultural y lingüístico defensa y promoción de valores cívicos y de la convivencia son los objetivos a perseguir lo contrario de la manipulación que usted denuncia señor maneiro no es cierto señor maneiro que desde la llegada del equipo de maite iturbe a la dirección del ente público

habitual de funcionamiento ni tampoco que se haga uso de una exigencia excesiva en torno al euskera como también usted en otras ocasiones ha reiterado

lehentasuna ez ezik erakundea sortzeari buruzko legearen beraren exigentzia ere badira y no como usted dice que estamos formando a la ciudadanía vasca

qué es lo que tiene que hacer e i te be al margen del euskera le reitero que los criterios periodísticos y deontológicos propios del periodismo y una sociedad democrática

eta euskadiri ikasgeletan euskararen irakaskuntza zehazteko gaitasuna bermatzea lortu dugu en la disposición adicional treinta y nueve la lomce exige en general y en todas las etapas un tratamiento análogo de la asignatura de la lengua cooficial zuk esan duzun bezala y literatura con la asignatura de la lengua castellana y literatura

al resto de las pruebas que componen las evaluaciones finales en la comisión denunciamos las referencias normativas a la enseñanza de la asignatura lengua cooficial y literatura por ser de exclusiva competencia de euskadi el acuerdo propuesto consiste en reconocer que la exigencia legal de tratamiento análogo se refiere a equiparación

y no supone limitación alguna para determinar su carga lectiva dentro de los límites de la normativa básica asimismo se han alcanzado otros acuerdos que se refieren a los consejos escolares y otros tres acuerdos

en los centros docentes en consecuencia

el acuerdo suscrito sirve tanto para que nuestro sistema educativo no sufra merma alguna

y sin duda alguna recordará usted haberme oído en más de una ocasión hablar de esquivar salvaguardar y proteger lo que hasta ahora se ha conseguido

esto es lo que estamos haciendo pero además ello no impide que podamos seguir avanzando no disuade que podamos tomar en cada momento las decisiones que consideremos más oportunas

en beneficio de nuestro sistema educativo en este caso concreto en beneficio del euskera se trata por tanto de un buen acuerdo que nos protege y nos permite avanzar en el futuro

por ello el gobierno vasco está trabajando también en una tercera vía para impulsar un acuerdo educativo que otorgue una mayor coherencia y estabilidad al sistema educativo vasco

minimizar el impacto de esta ley transgresora a través de una vía que nos permite avanzar

nuestro alumnado y nuestra lengua eskerrik asko

señor lehendakari seguimos esperando seis meses después de que su grupo asumiera realizar un plan de empleo para la administración vasca

noticias del plan seis meses después de que compartieran el criterio que trajimos los socialistas al pleno sobre que hay que organizar el empleo público

para garantizar la prestación de los servicios públicos desconocemos todavía como quieren hacerlo

en este dos mil catorce solo constan anuncios de última hora

en el presente año teniendo en cuenta la fecha en la que estamos y en otro simplemente se ha dejado pasar el ejercicio es más hoy se le ha pedido por parte de mi grupo por parte de los socialistas vascos al señor consejero de salud que concrete cuándo van a convocar

que acaban de anunciar recientemente en los medios de comunicación y han sido incapaces de concretar para cuándo no han contestado simplemente

medio año después lo que sí hay es conflictividad en el sector público anuncios de movilizaciones unidad sindical para reprocharle a este gobierno su gestión en esta materia y menos trabajadores estables porque las jubilaciones e incapacidades

y sabemos que hay limitaciones por parte del gobierno central sí ya conoce que nosotros queremos superar estas limitaciones y les hemos pedido

mejorar la actual tasa de reposición que está ahora en el diez por ciento porque el nivel de interinidad en nuestra administración es superior a la media española le hemos escuchado quejas reiteradas por falta de disposición del gobierno de rajoy para escuchar de euskadi en el verano fue una constante mediática las cartas del lehendakari a rajoy pidiéndole verse con él y lo consiguió en septiembre a nosotros nos parece muy importante la interlocución entre ambos ejecutivos

el asunto de empleo público no lo sabemos realmente pero tampoco parece que haya sido

el pasado mes de mayo a preguntas de nuestro grupo el consejero admitió una única reunión en noviembre del año pasado del viceconsejero con el secretario de estado y una reunión al día siguiente en la comisión de coordinación de empleo público

dos mil trece hasta ahora no les hemos oído quejarse ni lamentarse ni informar en público o en privado de dificultades y todo el mundo sabe que ustedes son muy dados a explicar las negativas del señor rajoy por lo menos en los asuntos que le interesan al pnv esta es pues la situación medio año después del mandato parlamentario no hay ningún plan de relevo generacional

ninguna ope va a cubrir si quiera el diez por ciento permitido para reponer empleos el diez por ciento que ya era posible que ustedes y que ustedes lo han desaprovechado

que en vez de garantizar la reposición elimina puestos de trabajo los sindicatos por su parte denuncian la existencia de menos personal para prestar iguales servicios retrasan la culminación de la última convocatoria en osakidetza en el dos mil once por una cadena

en ese departamento al reinterpretar las bases de la misma no hay noticias de ninguna negociación abierta para mejorar las tasas de reposición

estamos preocupados porque la eventualidad la falta de previsión y la nula voluntad de este gobierno no solo lleva a perder eficacia en la prestación actual de servicios sino que la condicionará en el futuro recordamos los datos esenciales tenemos una administración joven de una media de cincuenta y tres años

esos empleados se jubilarán a su vez su alto grado de conocimiento de la función pública debe ir transfiriéndose a nuevas generaciones y a su vez

adaptarse a las realidades tecnológicas del siglo veintiuno y sobre todo a las nuevas necesidades de los ciudadanos

hablamos por tanto de necesidades sanitarias que cada vez son más si queremos garantizar el derecho a la salud a todos los ciudadanos en una sociedad que ha conseguido

más años y con más calidad hablamos de necesidades educativas que exigen llegar con eficacia a cada estudiante para que los jóvenes vascos acaben

trilingüe y tolerante que les permita estar preparados para la vida laboral hablamos de que desde la administración se atienda con rapidez

de todo eso hablamos cuando hablamos de empleo público de planificación y de relevo generacional y no se ha dado nada en estos dos años de su gobierno el plan de innovación pública que nos ha presentado no fija ni plazos ni objetivos la ley de empleo público ha soliviantado

los sindicatos sanitarios han emprendido movilizaciones y aumenta la interinidad en educación porque no se han cubierto la totalidad de las

las limitaciones de madrid son por tanto excusas quejarse de rajoy es pose ustedes no han aplicado siquiera los estrictos límites

en los que le permite moverse la legislación básica del estado y los presupuestos generales y de paso vuelven a incumplir el mandato

pasado y mi grupo parlamentario los socialistas vascos le preguntamos al señor lehendakari cuál es su plan dónde está

para hacer viable el relevo generacional por qué no ha convocado ni una ope en ninguno de los servicios esenciales a parte de la dudosa y conflictiva en radio euskadi

cómo piensa el gobierno cumplir el mandato parlamentario para garantizar de forma consensuada el relevo generacional en la administración vasca que mantenga la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora sánchez voy a pasar por alto creo que no tendría sentido

todas las inexactitudes y las gravísimas lagunas que han atravesado su

una selección de los datos que se pueden aportar en un debate como este que quiere usted plantear ciertamente muy parcial y sectaria pero no puedo dejar pasar creo que una

fin con un mínimo contraste con la información publicada en prensa no estoy hablando de la información que cualquier parlamentario o parlamentaria podría haber solicitado al gobierno no no de la información publicada en prensa que usted

ha dicho usted que no tiene constancia de que en la correspondencia cruzada existente o que se ha producido en el verano entre el lehendakari y el presidente del gobierno

se publicó en casi todos los medios de comunicación estaba a disposición de todos los periodistas todo el mundo la conoció o sea no ya cualquier parlamentario o parlamentaria mínimamente interesado todo el mundo pudo acceder a ella y hay un capítulo entero relativo a la función pública folio y medio

con un planteamiento distinto al de las tasas de reposición y más específicamente relacionado

lo sabe todo el mundo todo el mundo menos usted al parecer que ha venido a hacer una interpelación aquí

bien efectivamente como usted decía en esta cámara

proposición no de ley fruto de una iniciativa del grupo socialista pero que finalmente culminó en una enmienda transaccional suscrita por ambos grupos parlamentarios

en la que estamos hablando de una proposición no de ley se instaba al gobierno a dos cosas

pero distintas en esencia y autónomas la una de la otra primero se le instaba al gobierno a hacer un plan de empleo para la administración

y que se conciba básicamente para hacer posible el relevo generacional

y en segundo lugar se le instaba al gobierno a analizar recuerdo la literalidad de la expresión me parece muy importante

a analizar dentro del marco normativo vigente la posibilidad de convocar el año dos mil catorce se requería al gobierno por tanto a analizar la posibilidad no a convocar opes

porque efectivamente hoy es el pleno de las opes hay muchas preguntas sobre opes

desde semanas antes pero hoy se ha puesto de manifiesto que el gobierno tiene en cartera varias pasando por alto la imprecisión de la expresión porque las opes como usted seguro que sabe no se convoca

la ope se pueden convocar procesos selectivos uno o varios

yo creo que la pregunta tenía que haber sido más ajustada a la realidad en lugar de preguntar usted cómo piensa cumplir debería haber preguntado cómo está dando cumplimiento porque ahora voy a dar cuenta de lo que se ha hecho desde entonces en relación con

y en ambas se han dado pasos importantes y si usted no ha tenido conocimiento de ellos es una de dos o porque no lee la prensa o porque no ha expresado no ha manifestado el interés mínimo que puede expresar o manifestar un parlamentario parlamentaria de esta cámara que quiere saber cómo están las cosas porque preguntas de su grupo parlamentario recibimos todos los días a cientos

procura cumplir como le corresponde a un gobierno democrático con los requerimientos informativos que proceden de esta cámara

por lo que se respeta al plan de empleo en aquella fecha el diez de abril

estudiar la posibilidad de elaborar un plan de empleo que en aquel momento ya se había constatado que debía completarse con elementos no estrictamente relacionados o no exclusivamente relacionados con los recursos humanos además de la problemática de los recursos humanos entonces ya se constató

vinculado con la evolución del servicio público y de las demandas de los ciudadanos la gestión de los recursos humanos no puede disociarse de los problemas relativos a la organización y de los problemas relativos

para dar satisfacción a los ciudadanos esta comisión que insisto ya estaba constituida el diez de abril cuando se aprobó esta

a la que usted hace referencia es una comisión eminentemente técnica presidida por el viceconsejero de función pública en la que se integran además del director de función pública también el director de acima

por esa perspectiva que consideramos que era imprescindible incorporar a la gestión a la planificación de los recursos humanos que además de lo estrictamente relacionado con la función pública también

a la dimensión servicial de la administración y organizativa tenían que estar presentes ahí

de composición insisto eminentemente técnica siete de sus diez componentes forman parte de la elite funcionarial de la administración relacionado con estos dos ámbitos función pública recursos humanos y organización desde entonces se estableció una metodología de trabajo que ha consistido en reuniones efectivas y

los puntos de vista y unos y otros para hacer posible un contraste de pareceres y un debate imprescindible en este caso porque como usted bien ha hecho notar

de un plan de empleo meditado y consensuado no era una cosa

viene trabajando la comisión la comisión empezó con un diagnóstico

la comisión culminará sus trabajos probablemente este mismo año en torno al mes de diciembre y sobre la base de la información

ese plan de empleo que requiere la proposición no de ley

por todo esto a lo que quiero hacer referencia entre las propuestas del

que ya está trabajando sobre el material hay una relativa provisión y acceso ya que usted se refiere de manera especial a las opes porque hay otros muchos aspectos que

donde por lo que se refiere a la administración general plantean la secuencia primero concurso de traslados y después ope como la más aconsejable por eso el gobierno vasco sin necesidad de que el plan de empleo sea formalmente aprobado por el consejo de gobierno ha empezado y ha dado pasos

es propósito por tanto del gobierno en el ámbito de la administración general convocar antes de que concluya el año

a y b siguiendo la secuencia recogida en la propuesta técnica que

una ope una ope pero que no tenga relación con lógicamente con las categorías

una ope exclusivamente para los indefinidos por sentencia creemos que después de las conversaciones que tuvimos con el ministerio el año pasado

a una convocatoria exclusiva de este tipo para indefinidos por sentencia de cara

esto está en marcha están los servicios técnicos trabajando en ello y todo esto estas dos cosas se pueden hacer la planificación incluye ese programa en este año dos mil catorce lógicamente el desarrollo del concurso de traslados

del dos mil quince y las convocatorias anejas o vinculadas o derivadas de la ope relativa a los indefinidos por sentencia se llevarán acabo también a lo largo del dos mil quince sobre los demás sectores

fin cada consejero está dando cuenta de las suyas yo le he escuchado bien al consejero de sanidad y he oído

lo ha dicho esta mañana lo hemos escuchado todos si usted ha estado atenta ha dicho que no aquí pero en fin

la promesa de la administración central de retirar el recurso todavía no se ha materializado y que por tanto pende sobre la convocatoria la posibilidad de que se produzca una suspensión

señor consejero estoy perfectamente informada las contestaciones y todas las preguntas que se han mandado y que existen en esta cámara y leo la prensa y estoy también perfectamente informada de lo que sale en los medios de comunicación lo que le estamos pidiendo hoy es precisamente salir menos en los medios de comunicación más sacar y aprobar empleo público porque llevamos dos años sin que haya salido absolutamente o prácticamente nada y por otro lado le tengo que señalar que cuando se ha hecho la pregunta al señor

al consejero de sanidad no ha hecho referencia a ninguna fecha a lo mejor si usted dice ahora que es para dos mil catorce pues ahora sí tenemos fecha porque acaba de decir

a ninguna fecha por otro lado en lo más profundo de la caída económica el anterior gobierno convocó

fuimos casi los únicos en españa y desde luego las más numerosas no hubo problema legal alguno y las limitaciones eran exactamente

si con su gobierno no se han hecho es porque su gobierno no ha querido en la pasada legislatura las opes se convocaron o se aprobaron me da igual

cuando caían los ingresos públicos ahora se empiezan a recuperar esos ingresos entre otras cosas gracias a una reforma fiscal

hasta tiempos no muy lejanos y a la que aún le falta completar con ambición la lucha contra el fraude luego los recursos disponibles no son excusa ustedes incluso han puesto

por diversas torpezas porque se empeñaron en interpretar de una forma

para adjudicar las plazas y lograron enfrentar posiciones de trabajadores que legítimamente aspiraban a contar con un puesto de trabajo estable en la administración mezclando lista de aprobados y suspendidos con experiencia hasta que el tiempo

en el último instante las baremaciones generando incertidumbre de nuevo entre quienes ya tenían una plaza adjudicada que finalmente se les ha retirado hoy se activan movilizaciones en la totalidad del sector público administración general sanidad educación ertzaintza radio euskadi no les puede pillar de sorpresa ustedes lo han fomentado

el diálogo social ni siquiera en las mesas sectoriales solo después del anuncio de una movilizaciónhacen promesas que no concretan y además su borrador de ley de empleo público se carga la negociación colectiva

de momento ustedes deberían haber convocado ope en el presente año y no lo han hecho eso es la realidad y de momento ustedes siguen careciendo de un plan a medio plazo para garantizar el relevo generacional y de momento desconocemos

para superar el diez por ciento de la tasa de reposición señor lehendakari son dos años ya de gestión y de momento solo cartas

bueno algo hemos avanzado primero no había cartas segundo las cartas no se referían a temas de relativos a la función pública

y no ha tenido ocasión después para corregirlo ahora habla de solo cartas no está bien

me ha reprochado una cosa y la contraria porque en la primera intervención nos ha acusado de opacidad no sabemos lo que están haciendo ustedes no hacen nada y cuando le he dicho que este tema está en toda la prensa me dice usted

damos ruedas de prensa o no las damos primero me lo niega y después me reprocha lo contrario no se puede estar reprochando una cosa y la otra bueno

señor consejero de salud de esta mañana yo creo que ha sido clarísimas y me remito al diario de sesiones dos mil catorce la primera ope

no se convocan las ope se aprueban se convocan después los procesos selectivos que se llevan a cabo en el marco de las ope

de osakidetza la primera este mismo año y ha hablado de otra ope también que se convocará que esperamos que se haga en este

y muy específica claro usted entra ya en una dinámica de comparación con el gobierno anterior yo fíjese en la comisión en la que comparezco

no reivindiquen del pasado las cosas que hicieron conjuntamente en los gobiernos con el partido nacionalista vasco

pero aquel gobierno que dependía del señor basagoiti que dijo el gobierno lo formo yo yo tengo la llave es el único gobierno que ustedes reivindican solo ese me llama la atención porque hay muchas cosas que vienen de atrás muchas cosas que podrían ustedes reivindicar también en gobiernos compartidos con nosotros y nunca lo consigo

se circunscriben exclusivamente a la trayectoria que tienen con el pp en fin no sé que amor profundo existe ahí atrás pero algo existe que la querencia les lleva ahí el gobierno anterior efectivamente

la aprobó en dos mil once dos años después mucha prisa no se dieron en el ámbito de la administración general gestionaron una ope una ope efectivamente firmada por idoia pero no por idoia mendia sino por idoia zenarruzabeitia en el año dos mil ocho

los últimos flecos de esa ope todavía los he cubierto yo o sea he entrado después de ustedes a tomar posesión

de los últimos flecos de los procesos selectivos en el marco de la ope convocada por

la rapidez que se han dado ustedes y el modelo de referencia que constituyen yo no quería hacer referencia al gobierno anterior pero es que usted hace

que claro no tengo más remedio que hacer referencia a ello me dice usted usted va a incumplir o no va a incumplir las tasas de reposición en normas básicas del estado mire le recuerdo

y he asistido personalmente a las aprobaciones de los presupuestos generales del estado de la última década desde el año dos mil tres en todos y yo he visto que desde el año dos mil cuatro en los presupuestos generales del estado siempre han tenido tasa de reposición los socialistas nos han sido una excepción en esto

del cien por ciento a partir del dos mil ocho empieza a bajarse gobiernos socialistas presupuestos aprobados por gobiernos socialistas el año dos mil nueve baja al treinta por ciento el año dos mil diez al

después entran ya los populares y siguen se limitan a seguir la estela marcada por el gobierno socialista usted me dice yo no estoy de acuerdo con las tasas de reposición yo tampoco y menos aún con que nos las impongan desde madrid pero esto no es un invento del partido nacionalista vasco ni de este gobierno es un invento de los socialistas

usted me dice que en la pasada legislatura se saltaron las tasas de reposición

y aunque estableció tasas de reposición para todo el mundo permitió al gobierno

es de aplicación inexorable para todo el mundo ya hemos visto como se las gasta el gobierno central cuando hemos intentado hacerlo estamos intentando hacerlo